general electric medical systems enpresa amerikarraren filial frantsesak

señoras y señores consejeros lehendakari volvemos a tratar en este parlamento el asunto de las multas lingüísticas en este caso de la mano de eh bildu y en este caso para tratar de volver a implantarlas obviamente votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley y por lo tanto

cuestión ya en fecha veintisiete de mayo de dos mil diez y ante la inminente entrada en vigor de las obligaciones lingüísticas y las multas adosadas a ellas tuvimos que presentar una proposición no de ley urgente para pedir al gobierno vasco del señor lópez que se y actuara para impedir la entrada en vigor y por lo tanto la imposición de esas multas lingüísticas aquel gobierno del señor lópez ni siquiera se había enterado

para posponer la entrada en vigor de las multas lingüísticas y luego que modificara la ley para definitivamente suprimirlas el partido nacionalista vasco por cierto

a la vista de aquella proposición no de ley de upyd el gobierno vasco dictó el decreto doscientos cuatro barra dos mil diez que se limitaba a posponer un año la entrada en vigor

y un día antes de debatir una nueva proposición no de ley de upyd presentada por un servidor y a la vista de que el gobierno socialista seguía mirando las musarañas es decir el quince de junio de dos mil once el grupo socialista vía proposición de ley inició los trámites para suprimir las multas lingüísticas

se produjo tres años después de iniciada la legislatura y se produjo gracias a la acción política de upyd nos costó pero lo conseguimos

para defender el euskera pero sobre todo para defender

por tanto teniendo en cuenta lo que nos costó suprimirlas obviamente votaremos en contra de esta iniciativa de eh bildu que pretende recuperarlas en todo caso tal como reiteré la pasada legislatura ante la modificación legal impulsada por el gobierno socialista no bastaba

había que y hay que eliminar también las obligaciones lingüísticas que la ley sigue

lo procedente no era eliminar solo las multas lingüísticas sino eliminar tanto las multas lingüísticas como las obligaciones lingüísticas en el ámbito privado algo que el gobierno socialista del señor lópez no se atrevió a hacer además es absurdo que si hay derechos no haya obligaciones

no haya sanciones el asunto es que no existe tales derechos que algunos proclaman por tanto como no existen tales derechos

y por tanto tampoco debe haber sanciones como luego explicaré obligar a empresas privadas y comerciantes a utilizar el euskera en el desarrollo de su actividad económica supone una injerencia del estado en el ámbito privado de las personas y de las empresas contrario al principio de libertad de las personas y de las empresas

despropósito es una muy mala idea y además contraproducente tratar de imponer el euskera a golpe de medidas coercitivas multas sanciones o imposiciones y supone además una vulneración de derechos

y además se vulneran derechos por tanto no solo hay que impedir que la legislación recoja sanciones

habría que proponer modificar la ley o directamente derogarla para suprimir las obligaciones lingüísticas a las empresas privadas por las razones que he explicado

el gobierno vasco emite cinco razones para mostrar su criterio

da cinco razones para explicar su criterio desfavorable el primero de ellos viene a decir que ya contamos con normas legales y por lo tanto esta proposición de ley

respecto a la normativa vigente la tercera razón es que la proposición de ley restringe la progresividad actual la cuarta razón que

y finalmente y la más importante que a juicio del gobierno un sistema sancionador no sería lo más eficaz ni lo más incentivador para el fomento del euskera en el ámbito del consumo ni para el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras

el gobierno para mostrar su criterio desfavorable a la toma en consideración reivindica derechos que reconocen no pueden cumplirse en este caso derechos lingüísticos

el problema es que tales derechos no existen y por tanto esas obligaciones también deben suprimirse

tiene derecho a hablar en el idioma que considere pero en el ámbito privado no puede obligar a que se le responda en ese mismo idioma tan sencillo como esto

no existen esos derechos y por lo tanto no puede haber tampoco obligaciones

sanciones su posición en relación a la imposición de las sanciones es distinta evidentemente a la que defendió el partido nacionalista vasco durante toda la pasada legislatura en fin lo que tuve que escuchar por exigir la supresión de las multas lingüísticas por parte de la portavoz del grupo nacionalistas vascos parece que

de sanciones es una muy mala idea ahora quizás por razones electorales reconoce que no es ni lo más eficaz ni lo más incentivador

olvida lo principal que la imposición de multas lingüísticas vulneraría

no solo es ineficaz por lo tanto sino que vulneraría derechos en fin esto es en nuestra opinión lo que tenía que haber señalado el gobierno vasco como en alguna otra ocasión he señalado en nuestra opinión el euskera ha tenido o tiene

quienes trataron de prohibirlo y quienes tratan ahora de imponerlo esos

históricos del euskera y nosotros nos oponemos a ambos dos a quienes en un momento determinado de la historia trataron de prohibirlo y quienes ahora tratan de imponerlo

del grupo popular a la toma en consideración de esta proposición de ley

recordando los tiempos de la inquisición y hoy es verdad que él quiere ocupar ese papel quiere que hoy los de bildu

los nuevos inquisidores los inquisidores del siglo veintiuno por eso rememoraba aquellos tiempos de la inquisición

trayendo aquí un proyecto que efectivamente nos habla de imposición algunos se rasgan las vestiduras cuando se proponen políticas lingüísticas

y aquellas que critican la imposición la sanción y hoy

se basen en la imposición en la sanción y las multas un proyecto de imposición que pretende obligar

generar obligaciones no solo a las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos y las ciudadanas sino que pretende generar obligaciones

de las personas mediante las sanciones y las multas y además lo más grave sanciones multas

en su proyecto de ley se recoge la propuesta de señalar socialmente a aquellos que no cumplen con sus planteamientos de imposición

políticas que ustedes plantean serán señalados socialmente mediante una especie de triángulo de los judíos que se tendrán que colocar en la puerta de las empresas

eso es lo que plantean en su propuesta pretenden convertir un decreto controvertido

ley un decreto que fue retirado modificado por esta cámara que fue suspendido en su aplicación sancionadora ampliando las restricciones limitando los derechos de los castellano hablantes en nuestra comunidad

de aquellas personas que en el país vasco todavía no conocen

o en el ámbito de sus relaciones cotidianas sino aquellos que no lo conocen y yo quiero

según los datos oficiales si sumásemos los que se declaran euskaldunes euskaldun zaharras euskaldunberris aquellos que dicen que

nos quedan muchos otros aquellos que no conocen hoy todavía el euskera y a veces pensamos en álava donde

que dicen no conocer el euskera pero es que en bizkaia hay ochocientos cuarenta mil vizcaínos que no conocen el euskera y en gipuzkoa

guipuzcoanos que no conocen el euskera

los que dicen en gipuzkoa conocerlo pero hay trescientos mil que dicen que no lo conocen

de este pueblo y ustedes quieren limitar sus derechos

con esta proposición de ley además amplían los supuestos sancionables extienden su ámbito de aplicación y las obligaciones lingüísticas a todo tipo de empresas ya no hablamos aquí recuerdo cuando hablábamos de las grandes empresas y de las distribuidoras

aquí ustedes plantean obligaciones y sanciones para las grandes empresas para las pequeñas para las medianas

para las empresas que tienen menos de cincuenta trabajadores de las que tienen menos de diez trabajadores y de las que tienen menos de cinco trabajadores plantean ustedes también obligaciones y sanciones microempresas para los autónomos aquellos que en un plazo breve o se ponen las pilas o serán sancionados eso es lo que ustedes están planteando no hacen distingos

en este planteamiento extensivo de la imposición restringen además la progresividad y hacen tabla rasa

la realidad sociolingüística preexistente les da lo mismo

les trae sin cuidado ustedes hacen tabla rasa y quieren plantear

el mismo planteamiento sancionador y de multas en cualquier parte en cualquier rincón del país vasco atacan además frontalmente el bilingüismo y además porque plantean que se podrá etiquetar no solo

ustedes dicen que se podrá etiquetar en euskera y en castellano o solo en euskera ustedes dejan la puerta abierta para que en aquellas administraciones o en aquellos sitios

ustedes lo que pretenden es una imposición del monolingüismo que desde luego ataca frontalmente lo que ha defendido siempre la mayoría de esta sociedad yo no voy a entrar ni en descalificativos ni en nada yo simplemente le voy a decir que usted está en este caso

con su propuesta fuera de lugar fuera de tiempo que nosotros desde luego no lo compartimos que venimos aquí y que reafirmar para que ustedes no tergiversen nuestra posición y las palabras de aquellos que simplemente criticamos las políticas lingüísticas venimos a defender el euskera que queremos desde el grupo popular

y que creemos que además pueden ser más eficaces que creemos en el euskera para la convivencia y sin imposiciones y que defendemos el euskera sí pero como decía

un instrumento para la discriminación de ningún ciudadano en nuestro país euskera si

atendiendo a los datos reales de la pluralidad de nuestra sociedad

a la diversidad de nuestro país a las diferentes realidades sociolingüísticas de los territorios históricos

o gipuzkoa en materia sociolingüística euskera sí pero con transparencia desde luego sin clientelismos sin forzar a nadie para que nadie pueda utilizar

para rebajarlo a la cabeza del prójimo euskera para cohesionar

pero no para dividir el euskera para facilitar oportunidades no para limitar las oportunidades euskera facilitador no euskera

eso es lo que defendemos euskera sí sin imposiciones sin sanciones sin multas

euskera desde la libertad eso es lo que pretendemos y creemos que así se avanza es la manera

porque nos oponemos como siempre hemos hecho a la imposición de multas en relación al uso del euskera porque creemos que las sanciones perjudican al euskera y vulneran derechos

proposamen honekin azken finean isunak euskararen kontra doazelako porque los socialistas entendemos que el euskera es patrimonio de toda la sociedad vasca

al margen de ideologías orígenes y partidismos y por eso es importante que toda la legislación para su desarrollo y promoción se haga con consensos amplios buscando la pedagogía más que la imposición en eso es en lo que hemos basado toda la política lingüística durante los últimos veintitrés años de extensión y fortalecimiento

en el respeto a la libre elección de lengua y en el acuerdo sin el que nada hubiera sido posible

individuales que ha relatado antes pero sí firmemente el panorama agónico al que se ha referido al que nos ha dibujado por que no es real

el consejo asesor del euskera establece como condición necesaria para el desarrollo del euskera la adhesión por parte de la ciudadanía porque por encima de todo

y sin embargo hoy bildu propone sanciones que nos llevan en el sentido contrario en el

porque las multas no tienen nada que ver con la realidad sociolingüística

el trece por ciento de los vascos el trece por ciento declaran que

nos opusimos firmemente en dos mil tres a las sanciones a las empresas privadas durante el debate de la ley que hoy está en vigor también lo hicimos en dos mil ocho

de hace dos legislaturas aprobó un decreto que regulaba esas sanciones y por lo mismo el dos mil doce trajimos a este parlamento una proposición de ley que al ser aprobada

y hoy tres años después seguimos defendiendo lo mismo

que favorezcan el avance del euskera siempre progresivamente de acuerdo con la realidad sociolingüística y evitando perjuicios a las personas lo mismo que dice el documento euskera veintiuno que consensuó el consejo asesor del euskera y que apuesta por la progresividad la flexibilidad

por evitar imposiciones por evitar forzar las situaciones y tampoco los sindicatos están por la labor de la imposición

firmaron hace dos legislaturas y a un acuerdo de colaboración con el gobierno vasco para la normalización del uso del euskera en el mundo de la empresa

ninguna en la imposición o la obligatoriedad pero sobre todo es incuestionable que las nuevas generaciones incorporan el euskera en el sistema educativo hasta el punto de que los niños y niñas que se han matriculado de este curso en infantil y primaria

de la matrícula y ese es el futuro de forma natural nuestros hijos llevarán el euskera a los puestos de trabajo por qué entonces ese empeño

queremos que el euskera sea únicamente una lengua de las instituciones o una lengua querida por los ciudadanos los socialistas tenemos clara la respuesta

igual que hemos defendido con la misma firmeza que las administraciones públicas deben atender a cada persona

arreta eman behar diotela pero la iniciativa que presenta bildu hoy aleja del euskera a las personas por las multas y porque ataca el bilingüismo ya se ha dicho

que cualquier comunicación escrita sea al menos en euskera olvidándose del castellano nuestra otra lengua oficial

coincidimos en general con las razones que expresa el criterio del gobierno en realidad

para justificar la eliminación de las multas la pasada legislatura y que ahora el gobierno adopta bienvenidos a esta senda aun así tenemos una discrepancia en ese criterio del gobierno y es la razón número seis discrepamos porque defiende la modificación de aspectos básicos de la regulación del euskera mediante

y una cosa es aprobar leyes que amplíen o complementen la ley del euskera del ochenta y dos y otra a través de esas leyes modificar de hecho la ley del euskera los socialistas consideramos imprescindible que si se modifica algún aspecto de la ley del ochenta y dos se haga modificando esa ley directamente y llegando el mismo consenso que tuvo

no andamos tan sobrados en euskadi de consensos básicos como para romper el del euskera

de que se encierren en sí mismos ofendidos y dolidos así he entendido el inicio de su intervención solo recuerde lo que dijo mitxelena un nacionalista importante un lingüista muy importante y al que le preocupaba mucho el euskera dijo no debemos caer en el infierno del gueto por huir del purgatorio de la diglosia no lleve usted ahí el euskera gracias

yo le pediría una cosa que no hable en nombre de todos los euskaldunes esto para empezar

es que los euskaldunes son muchísimo más razonables que usted

mucho más razonables que usted la sociedad vasca es mucho más razonable que usted en lo que se refiere a la política lingüística yo creo que lo que se evidencia de su intervención de hoy y de sus habituales intervenciones es que

no conoce euskadi no conoce la realidad sociolingüística de euskadi no cree en la sociedad vasca

pero es que tampoco cree en la sociedad no tiene confianza en la sociedad y esta es una proposición que claramente ataca al euskera y ataca

porque a usted no le gusta cómo se comporta de manera natural la sociedad vasca y por lo tanto a través de imposiciones y sanciones quiere corregir su habitual comportamiento y esto es lo que se deduce de su iniciativa y de todas las iniciativas que presenta que no cree en la sociedad vasca está usted obcecado está usted obsesionado

esa obsesión por corregir el comportamiento lingüístico de la sociedad vasca relájese que es algo que habitualmente le digo le va a sentar mal confíe más en la sociedad vasca hombre y reconozca también los avances que se han producido en las últimas décadas en relación al uso del euskera en nuestra comunidad y el avance que ha tenido el euskera en nuestra comunidad

para el impulso y el fomento del euskera reconozca disfrute usted de vez en cuando

y eso es lo más triste y además con esta iniciativa lo que pretende no es ya limitar el acceso de los ciudadanos al empleo público sino ahora también

de los ciudadanos al empleo privado y es muy mala idea señor isasi por lo tanto en fin nosotros defendemos

y nos oponemos a las imposiciones a las sanciones a las multas amaitu da denbora y a sus obsesiones simplemente eso nada más y gracias eskerrik asko

se trata ya de repetir los argumentos pero creo que necesitamos insistir señor isasi nosotros desde luego rechazamos cualquier norma que

creemos que ese no es el camino que desde luego el euskera no puede avanzar con políticas de imposición rechazamos

nuevamente aquí que rechazamos cualquier tipo de discriminación por motivos lingüísticos en la relación de la ciudadanía con cualquier administración

que también se relacione con las administraciones públicas hablaba antes de

para la convivencia sin imposiciones hablaba de justicia sin discriminaciones de atender a la realidad esa realidad de la que le hablaba usted quiere limitar el derecho de los vascos que viven en castellano que solo conocen el castellano hoy y sigue usted sin reconocer que esta sociedad está haciendo un esfuerzo

en el conocimiento y en el uso del euskera pero todavía hay un millón y medio de vascos en nuestra comunidad que no conocen el euskera y usted quiere limitar sus derechos con esta ley usted limitaría sus derechos con esta ley sí porque usted ataca directamente

se entromete en sus relaciones privadas en las relaciones privadas de la ciudadanía nosotros eso lo rechazamos y creemos que es bueno denunciar las políticas de imposición ahora que nos encontramos delante de unas elecciones lo hacemos porque allí donde gobierna bildu o allí donde el partido nacionalista vasco está condicionado por bildu en los gobiernos

políticas de imposición de sanción y de multas lo vivimos en el pasado

que imponía sanciones era un decreto no de bildu era un decreto del pnv

alertamos hoy porque hay unas elecciones dentro de un mes que aquellos sitios

o aquellos gobierno impulsado por bildu o condicionados por bildu

tendrán la tentación de volver a las políticas de la imposición de la sanción y de multa tenemos ya casos contrastados en municipios de gipuzkoa ustedes no respetan el bilingüismo no

los dientes fueran diferentes según la ideología pero bueno si es así efectivamente nosotros

pero a otros ustedes por ejemplo además de uñas y dientes nacionalistas españoles tienen excluyentes y antidemocráticos señor

dejen de decir falsedades el decreto anterior del dos mil ocho las sanciones no estaban desarrolladas solo se recogían la referencia legal

el gobierno anterior lo que hizo fue en cuatro años relajarse y además proyectar a la sociedad una idea de que

por eso ha sido el grado de cumplimiento del decreto tan bajo

con los ciudadanos y los agentes implicados ganbara honetako edozein taldek aurkez dezaken nahi duen edo

señor lehendakari señora consejera durante los casi tres años que llevamos de esta décimo legislatura en este parlamento hemos hablado en varias ocasiones

unos para su paralización como es el caso de hoy otros para incentivar su construcción por ejemplo en mi primera intervención en esta tribuna en dos mil trece fue motivada no de ley presentada por el señor oscar matute de eh bildu

a que no se destinara ni un solo euro del presupuesto del dos mil trece a financiación del tren de alta velocidad

prevista para dicho proyecto a garantizar los servicios públicos

porque el dinero destinado a la construcción de la y vasca se realiza

que lo que hace es detraerlo de la aportación del cupo vasco por lo tanto es un dinero finalista que si no se destina a la realización de esa obra

que tenemos representación en este parlamento ya nos posicionamos a favor de esta infraestructura ustedes fueron los únicos que votaron a favor de una proposición no de ley que pretendía paralizar el tren de alta velocidad mientras que el partido nacionalista vasco el partido socialista el partido popular y upyd firmamos una enmienda transaccional que

del tren de alta velocidad por cierto enmienda transaccional que literalmente hemos traído como enmienda a la totalidad por parte del partido socialista pero como eh bildu no tuvo

porque ustedes son tan intolerantes que no respetan que pueda haber mayorías que no sean las que ustedes representan

que opinar diferente es un derecho en democracia pues ustedes siguen

y volvieron a presentar una moción con secuencia de interpelación sobre las macroinfraestructuras en aquella ocasión otra vez el señor oscar matute instaba al gobierno

para la realización de las obras del ramal guipuzcoano del tren de alta velocidad pero también instaba al gobierno de españa a que no continuara

mientras que el resto de las formaciones volvimos a juntar nuestras fuerzas para aprobar una enmienda transaccional mediante el cual el parlamento volvía a mostrar su respaldo a la construcción del tren de alta velocidad en euskadi

estratégica para el desarrollo económico y modernización de nuestra comunidad autónoma pues bien hoy otra vez más ustedes continúan sin respetar

de esta cámara respecto a la y vasca y vuelven a presentar otra vez una moción con secuencia de interpelación para su paralización esta vez ya no es usted señor matute ahora se lo ha pasado al señor maeztu vuelven ustedes a solicitar la paralización provisional de las obras

recomendada por la comisión europea la realización de un análisis detallado de coste beneficio que tenga en cuenta la socioeconomía actual

este análisis porque si se hiciera el resultado del mismo fuera el que fuera a

les da igual el resultado que pudiera ocasionar y continuarían torpeando el progreso de euskadi

estudios sobre la alta velocidad que sus resultados coinciden

pero no han traído autores de otros estudios que reflejan los beneficios económicos sociales y medioambientales que pueden traer a euskadi

en la enmienda transaccional que hemos alcanzado entre el partido nacionalista vasco el partido

el partido socialista y el partido popular hemos solicitado al gobierno vasco que traiga a esta cámara todos los informes y estudios que disponga la comisión europea el ministerio de fomento y adif relativo a esos análisis de coste beneficio que ustedes tanto reclaman y que dicen que no existen

ustedes tienen un cuestionamiento claro al respecto señor maeztu y desde el partido

pero igual le pedimos que ustedes respeten que la mayoría de esta cámara es favorable al tren de alta velocidad es favorable un proyecto estratégico para euskadi un proyecto que nos sitúa en el mapa

que interconecta nuestras capitales nos conecta con el resto de españa y europa y es una infraestructura irrenunciable para nuestra articulación como una sociedad del siglo veintiuno

que cumplamos con las recomendación que nos hace la comisión europea de elaborar un análisis coste beneficio

que respeten una infraestructura como es la y vasca que la propia comisión europea ha incorporado

en concreto en el eje corredor atlántico europeo porque esa misma comisión europea que ustedes nombran también apuesta por esta infraestructura aportando fondos económicos europeos hace bien poco el presidente de la comisión de transportes y turismo del parlamento

pertenece al grupo lo verdes todo hay que decirlo en su visita a las obras dijo la y vasca no es un proyecto regional esta infraestructura nos

a lisboa pasando por parís y madrid nuestra misión desde el parlamento europeo es luchar porque en estos proyecto transfronterizos claves para la unión europea

y respeten de una vez por todas que hay una mayoría social en euskadi
que es favorable a la red ferroviaria vasca muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

egun on buenos días gracias presidenta señor maeztu nos pide usted en esta moción

instemos al gobierno vasco a paralizar mínimo seis meses las obras del tren de alta velocidad y mientras tanto encargar a un grupo de investigación un análisis

el informe hacer un pleno monográfico para poder llegar a un acuerdo lo más

al parecer el acuerdo que ya existe y que se ha manifestado en infinidad de ocasiones no le parece suficiente o no lo tiene en consideración le voy a leer unas expresiones a ver cómo le suenan rigurosos análisis coste beneficio versus informes

sobre supuestas repercusiones económicas directas de una inversión pública de cantidades ingentes de dinero público esos informes hechos a gusto del que paga esas palabras son suyas

realizadas en la interpelación que ha dado origen a esta moción con semejante ánimo

a ningún informe o ningún estudio de ningún experto con la actitud debida

como poco prejuiciosas que es lo mismo que decir que usted tiene una opinión de una opción previa

a cuyo conocimiento se aproxima solo en la medida en que este conocimiento retroalimenta su opción y su opinión a petición de la

concretamente para dar su opinión sobre la rentabilidad económica y social del tren de alta velocidad vaya lo que usted está pidiendo ahora acabamos de tenerlo no sé si

es cierto que como conclusión general arrojaron dudas derivadas de sus investigaciones sobre la rentabilidad económica y social del tren de alta velocidad pero señor maeztu no fueron tan categóricos y tan maniqueos como a usted le hubiera gustado y además

a las áreas de conocimiento de sus disciplinas cuando son muchos más los aspectos que habría que tener en cuenta es más releyendo

las comparecencias incluso apuntaban a aspectos que eran positivos y que usted lógicamente siempre omite

animo a que lo vuelva a leer porque existen también aspectos positivos marcados por ellos pero que no

pero bien si tuviéramos que simplificar y resumir la conclusión que ustedes sacaron de esos estudios es que estos expertos estaban en contra del tren de alta velocidad supongo que por esa misma

razón esa misma tarde ambos comparecientes fueron invitados y participaron en la charla

que euskal herria necesita organizado por la coordinadora

en bilbao vamos que usted les escuchó dos veces el cuatro de marzo sección continua como en el cine de pequeños pero seguro

no le parecería tan interesante asistir por ejemplo a las jornadas que también se hicieron en bilbao poco antes organizadas por la cámara de comercio sobre el tren de alta velocidad en euskadi nuevas oportunidades para la actividad turística pero esas conclusiones esas no las saca vale

las terceras jornadas internacionales sobre nuevas tecnologías en el sector ferroviario organizadas con el gobierno vasco y la unión internacional de ferrocarriles seguro que tampoco fueron todas las conclusiones de su gusto

y qué opina usted de los análisis y estudios de la comisión europea del ministerio de fomento de adif relativos a los análisis coste beneficio o la rentabilidad económica y social

incluido dentro del estudio informativo del impacto económico en la comunidad autónoma vasca

son informes a doc hechos al gusto del que paga es importante que hoy se visualice en esta cámara un respaldo inequívoco aunque no sea unánime una vez más al tren de alta velocidad

y es muy importante porque estamos en la antesala de unas elecciones municipales y forales que podrían confundir al ciudadano por eso los grupos que hemos

a la totalidad su iniciativa hemos alcanzado un acuerdo que mande un mensaje claro a los vascos el parlamento vasco

y se van a cumplir los compromisos y en lo que al partido popular corresponde

no admite discusión seiscientos millónes de euros de media en lo que llevamos de legislatura gobernando en españa presupuestos generales del estado y boletín oficial eso es lo que cuenta voluntad determinación seriedad pero sobre todo
lo hechos y yo a los hechos me remito gracias eskerrik asko

aunque parezca mentira son unos estudios que se centran en la realidad del estado

pero a los que sí queremos hacer unas consideraciones ya que muchos de los parámetros utilizados en el cálculo de los informes son como poco dudables en relación con los ingresos se tienen en cuenta los ingresos por peaje es decir el canon por utilización que paga renfe a adif pero no se computan como ingreso otros ingresos generados

el alquiler de las instalaciones el uso de estaciones y los locales comerciales y el canon es la mitad de los ingresos que tiene adif en estos conceptos

pero que en españa en el estado español actualmente las líneas tienen un incremento anual de un diez por ciento de usuarios tampoco reflejan estos estudios los costes evitados

para cubrir estos tráficos se comparan incluso realidades diferentes a nivel europeo

existe una red convencional comparable con la francesa o la alemana con unas velocidades medias muy altas

como tanto como en alemania como en francia es utopía

ni que todo tenga que ser alta velocidad concluyen también esos estudios que la inversión en alta velocidad se hace a costa de la red convencional que se abandona

de que estos estudios no reflejan la realidad vasca en la comunidad autónoma vasca desde dos mil seis año en el que se firmó la encomienda de gestión hasta dos mil catorce se ha invertido prácticamente lo mismo en mejoras de la red existente competencia de las administraciones vascas

se han invertido mil quinientos quince millónes de euros y en la red convencional operada por eusko tren

trescientos cuarenta y cinco millónes de euros más es decir mil quinientos setenta y seis millónes de euros además

en la red de cercanías operada por renfe los beneficios sociales no se incluyen en la cuenta social de beneficios de explotación eso sí se contemplan los gastos de explotación

estos datos y otros reflejan que en estos estudios también hay lagunas además hay otro dato que llama poderosamente la atención de la lectura de las conclusiones de los últimos estudios publicados por fedea

y que además sus ingresos aunque no contabilizan todos cubren los gastos de explotación es decir según estos autores las infraestructuras ya construidas puede que no vayan a recuperar

tales afirmaciones son puestas en duda por algunos de los estudios de estos autores en el corredor atlántico

del otro por qué se cuestiona con más contundencia una línea que la otra

del eje mediterráneo tenga influencia en estas afirmaciones teniendo en cuenta quienes son los patronos

repase un poco los patronos de fedea para hacer alguna lectura más de la que hace amaitzeko beharrezkoa da inbertsio publikoak egin aurretik ebaluazioak egitea

sí gracias presidenta brevemente para explicar cuál es la posición de upyd en relación a la moción original y a la transaccional que el resto de grupos han firmado y cuál es la razón por la cual votaré lo que

vamos a votar en contra de la moción planteada por eh bildu no vamos a apoyar que se paralicen provisionalmente las obras del tren de alta velocidad no nos negamos

o tampoco vamos a posicionarnos digamos en contra o no tenemos nada en contra que pudiera celebrarse un pleno monográfico sobre la cuestión

muy interesante pero evidentemente no vamos a apoyar una moción que lo que fundamentalmente pide es la paralización de unas obras que ya están en marcha nos parece que pedir eso a día de hoy es efectivamente un imposible y pensamos

adelante y que tienen que finalizarse en relación a la enmienda de transacción firmada por el resto de grupos en el caso de que se permitiera votar por puntos nosotros apoyaríamos el primero de los puntos y el cuarto pero no apoyaríamos ni el segundo ni el tercero nosotros no vamos

a ningún gobierno que acorte plazos en relación a esta infraestructura no vamos a hacerlo nos parece que hay asuntos más urgentes que este pensamos que es urgente atender a las personas que más están sufriendo la crisis

el asunto relacionado con las ayudas sociales nos parece que es más urgente atender a las personas en riesgo de exclusión social nos parece que es mucho más urgente mejorar la educación nos parece que es mucho más urgente mejorar la sanidad nos parece que es mucho más urgente apoyar la inversión

debe hacerse lo que se refiere a las obras en euskadi deben terminarse pero en opinión de upyd no debemos instar a ningún gobierno

no nos parece que sea un asunto prioritario por lo tanto no estamos ni con los que proponen paralizar y abandonar las obras del tren de alta velocidad en euskadi ni tampoco con los que durante largos años han derrochado dinero público

en esta infraestructura en muchos casos por razones exclusivamente electoralistas o

priorizando tramos absolutamente innecesarios por simples intereses electorales o partidistas o para beneficiar a determinados alcaldes o a determinados gobiernos

más fuera de euskadi que dentro especialmente fuera de euskadi es así como se ha actuado y por lo tanto no vamos a apoyar esa forma de hacer política

los puntos números uno y cuatro de la propuesta de transacción no vamos a apoyar que se pida a ningún gobierno que se acorten plazos

deben seguir adelante deben finalizarse y pedir a día de hoy que se paralicen nos parece que es un imposible gracias eskerrik asko maneiro jauna

en primer lugar y como única mención al señor zaballos decirle

esta mañana y ha visto el titular de que desde madrid le dicen

popular entonces hoy ha tenido que salir usted especialmente agresivo hacia euskal herria bildu pero de ahí a tener que

intolerantes por traer a un parlamento un tema

me parece que hay un trecho bastante grande no nos da no solo usted nadie ningún dato para rebatir lo que está saliendo

miles de millónes de euros en una infraestructura que no tiene ninguna rentabilidad social

es que esto lo paga madrid mentira esto lo estamos pagando entre todas y todos los vascos por ahora lo pagamos entre todos y todas los vascos que es cierto que existe una encomienda de gestión sí que es cierto que el dinero no está llegando también porque la

por lo tanto no sigan utilizando datos que son mentira pero el mayor esfuerzo y el mayor papelón ha sido el de la señora vaquero el de querer darle un label vasco al tren de alta velocidad como si esto no tuviera nada que ver con la planificación de alta velocidad del estado español

en el plan de infraestructuras de transporte del estado español desde hace diez años como

que la y vasca al igual que el resto de la alta velocidad en el estado español se haya hecho

todas las capitales de provincia con madrid desde esta visión centralista quién es quien españoliza la política vasca euskal herria bildu ustedes están fomentando una línea de alta velocidad diseñada para unir todas las capitales de provincias con madrid ustedes son los que están haciendo

la pregunta es va a ser rentable económica y sociablemente el tren de alta velocidad

pero es que todos los datos nos hacen hacer esta pregunta

rentable un informe que dice que la unión de alta velocidad entre provincias que triplican el número de habitantes a lo que tiene el conjunto de la comunidad autónoma vasca no es rentable no se recupera ni la inversión y es deficitario la explotación me pueden decir ustedes cómo van a hacer rentable la línea de alta velocidad el número de usuarios

me pueden decir dejar de decir la palabra estratégico y darme datos y darle a la ciudadanía datos

o es que van a ser un metro entre tres capitales es que vamos a gastarnos más de seis mil millónes de euros para dar servicio al uno por ciento

esa es la fórmula secreta del tren de alta velocidad hacer un metro entre las tres capitales gastarnos más de seis mil millónes de euros para dar ese servicio

su política de infraestructuras es la misma que se hace en españa política de inversiones faraónicas

solo para los bolsillos de unas pocas empresas eso es lo que se lleva haciendo en españa

autónoma vasca en españa ya sabemos a cambio de qué se hace esa política hemos visto cómo se han pagado sobrecostes injustificados cómo se están inflando gastos injustificados al igual que se está haciendo aquí en la comunidad autónoma vasca

sobres de donativos para financiar a los partidos políticos

a ustedes dentro lo que va es el último informe que ha sacado la comisión europea último informe

para las líneas de alta velocidad y para el resto de inversiones léanselo miren lo que dice este informe y vean que no hay

que tenga el gobierno vasco que siga los criterios de coste beneficio que recomienda la comisión europea seguramente esperarían encontrar otra cosa dentro de estos sobres yo creo que la ciudadanía vasca va a agradecer mucho más

muchas gracias señora presidenta en primer lugar señor dani maeztu el partido socialista respeta en esta cámara

e incluso que las propias iniciativas que nosotros presentemos sean rechazadas lo respetamos

cuando digo que ustedes son intolerantes es que siguen siguen y siguen y siguen esperando que la única solución de cortar esta campaña

es que aquí salga una iniciativa que sea favorable a sus posicionamientos

porque hay otras mayorías y tienen que respetar hay otras mayorías que pueden opinar diferentes que ustedes eso es la democracia

no son rentables ninguna dígame usted tanto que habla de estudios de coste y beneficio qué línea de transporte es rentable

análisis coste beneficio no tendríamos ni metro bilbao ni metro donostialdea ni tranvía de vitoria

no tendríamos ninguno ninguno porque ninguna línea de transportes es rentable

se opusieron se opusieron se opusieron y ahora me gustaría saber por dónde van ustedes a navarra y me gustaría no tengo ni idea señor maeztu no le puedo decir en qué fecha

a euskadi pero sí que en el caso que a usted yo le vea

es que no hay vagón suficiente para que echen a correr y por último al señor

maneiro de upyd ustedes dicen que votará a favor del punto uno y cuatro y la abstención del dos y el tres me sorprende

de la enmienda transaccional que usted mismo firmó y votó y en ningún momento

sino que se cumplan los que están y que los órganos competentes por lo tanto ustedes hace dos años votó esto a favor
me sorprende que ahora se abstenga muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

en esta tribuna eso no le arroja ni más razones

se va a demostrar volviendo a su iniciativa por mucho que también nos ignore en su turno de réplica como si el partido popular no tuviera nada que ver

le diré que el partido popular

invertido en lo que va de legislatura dos mil trescientos millónes de euros en esta infraestructura y eso

el ritmo inversor del gobierno de españa es de seiscientos millónes de euros por año y en este ritmo está la determinación este presupuesto es el que va a permitir que dentro de cuatro años podamos contar con esta infraestructura finalizada a los hechos me remito como ya

hasta astigarraga y se han finalizado obras en tres tramos y está previsto que se finalicen otros seis

tres de las cuales se concluirán en dos mil quince este semestre

se han iniciado las obras de la plataforma del tramo mondragón bergara

y así podría continuar con hechos señor maeztu con lo cual

no vamos a votar su moción y por eso hemos acordado con el resto de grupos enmendantes

un texto que deje claro y que haga inequívoco una vez más la voluntad de esta cámara que no será unánime pero sí que es mayoritaria sobre la importancia que le concedemos a esta infraestructura

ya digo que era importante simbolizar hoy en este acuerdo ningún tipo de fisura entre quienes apostamos

vasca porque es cierto y se lo ha recordado

que estamos en precampaña y en campaña y se corre el riesgo de que discrepemos en algún

pero lo fundamental se va a demostrar hoy una vez más con la enmienda que hemos acordado los tres grupos gracias

sí de manera breve para contestar al señor zaballos puesto que ha señalado que le sorprende mi posición

es la posición más sensata y más razonable

consideramos que efectivamente este parlamento debe apoyar la construcción de la nueva red ferroviaria de euskadi que forma parte del corredor ferroviario transeuropeo de carácter prioritario madrid vitoria dax y no tenemos ningún problema en que se pidan

tal como se realiza y se propone en el cuarto punto pero no vamos a pedir a ningún gobierno ni que cumpla plazos ni que los acorte ni vamos a decir a ningún gobierno que esta infraestructura es urgente indispensable o prioritaria porque no nos lo parece en absoluto nos parece que lo prioritario teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra

es atender a las personas y a los ciudadanos que peor están sufriendo la crisis y aquellos ciudadanos que se encuentran en peor situación por lo tanto

y el gasto social por eso nos vamos a abstener en los puntos

muchas cosas mal en relación en relación al ave en españa

de modo diferente pero en todo caso no vamos a pedir ni que se cumplan unos plazos que algunos han establecido ni que estos plazos se acorten no nos parece que esta infraestructura sea prioritaria al fin y al cabo no podemos olvidar que esta infraestructura

una pequeña parte de la sociedad y no precisamente esa parte de la sociedad que se encuentra en peor situación

septiembre del año dos mil veintiocho cataluña celebra el décimo aniversario de su independencia mientras tanto en las campas de foronda el candidato a lehendakari por el partido nacionalista vasco

bakoitza queremos claridad y concreción queremos compromisos y los queremos compromisos claros y concisos

está demandando es lo que la ciudadanía está demandando que le hablemos claro sobre cuál es el objetivo de cada cual pp

eta berak esan du bilatu behar dugula ahalik eta adostasunik zabalena berak esan du acuerdo incluyente y que ese acuerdo incluyente tiene que contemplar

soka motza izatea el partido socialista está cada vez más atrás en este tema el partido socialista de euskadi está por detrás incluso de ramón

y aun y todo van a seguir estando cada vez más atrás porque entienden que la función política fundamental que les corresponde en este tiempo político es ser la cuerda que ata al pnv para que el pnv no vaya hacia adelante

con el partido socialista en ese acuerdo no va a estar el derecho a decidir y queremos saber si ese es el acuerdo que quiere el partido nacionalista vasco

estatus politiko berri batetaz hitz egitea erabakitzeko eskubiderik gabe queremos el derecho a decidir y lo queremos porque queremos decidirlo

y creemos que no hay un nuevo estatus político si no hay derecho a decidir si no contempla el ejercicio del derecho a decidir queremos entre otras cosas poder decidir las relaciones con el resto de territorios vascos queremos poder definir poder decidir cuáles son las relaciones que queremos tener con el resto de ámbitos jurídico administrativos de euskal herria queremos también poder decidir el nivel competencial que nos vamos a dar y también queremos decidir por supuesto

con el estado español y para nosotros y para nosotras para quienes formamos eh bildu el único límite es la voluntad popular

argi eta garbi hitz egin dezagun a buen entendedor pocas palabras bastan dice un refrán en castellano y nos da la impresión

es precisamente todo lo contrario es cuantas más palabras mejor para que se entienda lo menos posible pedimos claridad pedimos concreción

edo ez den horrela izango esta pregunta la queremos hacer porque cada vez que la hemos hecho

teniendo en cuenta la importancia que van a tener las próximas elecciones forales y municipales

preguntamos alto y claro los gobiernos municipales y forales que surjan de esas elecciones van a ser todos gobiernos a favor del derecho a decidir

porque si se hacen con el pse o si se hacen con el pp

gobiernos en contra del derecho a decidir y por lo tanto pedimos claridad y concreción en esto también claridad

presidenta en fin es obvio que nos encontramos ante un debate que plantea eh bildu y que tiene un único destinatario

es la batalla nacionalista es la guerra fraticida entre nacionalistas el objetivo de eh bildu es

al partido nacionalista vasco sumirle en sus contradicciones dejarle en evidencia ese es el objetivo evidente y a nosotros en fin no nos parece mal que eh bildu trate de meter el dedo en el ojo al partido

no nos parece mal que eh bildu exija concreción y claridad al partido nacionalista vasco nosotros también se lo exigimos al partido nacionalista vasco concreción y claridad que diga exactamente qué es lo que quiere por lo tanto a nosotros no nos parece mal que aquí cada grupo político plantee cuáles son sus propuestas y que

trate de atacar a un partido u a otro dejándole o tratando de dejarle

luego tendrá o no la capacidad de resolver esa guerra fraticida en este caso entre nacionalistas yo evidentemente voy a intentar ser

posible y creo que nuestra enmienda de totalidad es suficientemente clara y esta enmienda de totalidad lo que pretende sobre todo

cuáles son las reformas que upyd plantearía en relación a la constitución española o en relación al modelo de estado o en relación a eso que se llama el encaje

delimitar el campo de juego recordar cuál es el campo de juego recordar cuáles son las reglas a las que debemos ajustarnos explicar cuáles son

en nuestra democracia y por eso hemos planteado la enmienda que hemos presentado porque nos parece fundamental sobre todo en aquellos parlamentos donde hay mucho nacionalismo

de la democracia que disfrutamos y por eso proponemos que este parlamento recuerde que cualquier decisión sobre el modelo territorial del estado y la propia constitución española corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y que debe llevarse acabo a través de los procedimientos legales

como digo ni siquiera décimos cuál es nuestra propuesta en relación al modelo de estado esto vendrá más adelante dentro de algunos plenos lo que hacemos es delimitar el campo de juego

recordar por lo tanto al conjunto de la cámara y a la sociedad que hay unas normas que hay unas reglas que hay unas leyes que todos sin excepción debemos cumplir sea o no apoyada por este parlamento

o guste menos al conjunto del nacionalismo el modelo territorial del estado el futuro del país la reforma o no de la constitución española corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles el derecho a decidir sobre estas cuestiones al conjunto de la sociedad española ha habido algún representante político que en los últimos tiempos ha venido a decir que el derecho a decidir no existe sí existe pero está basado en las competencias que tiene cada administración cada comunidad autónoma o cada país y en este caso decidir estas cuestiones hay que decir que el derecho a decidir corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles el derecho a decidir en relación al futuro del país

corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles bajo ningún concepto una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del estado

excluyendo al resto de dicha eventual decisión ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio

que la constitución reconoce y garantiza a todos y cada uno de los ciudadanos españoles en un estado social y democrático de derecho nadie está por encima de la ley

ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional que no es otro que el conjunto de los ciudadanos único que puede ejercer por los cauces legalmente establecidos

sobre la unidad del país y los derechos del conjunto de los ciudadanos y esto es objetivamente así y del mismo modo que si upyd quiere reformar

debe proponer hacerlo a través de los procedimientos legales establecidos y respetando lo que diga este parlamento

como eh bildu como cualquier otro grupo si quieren reformar la constitución o cambiar el encaje de euskadi en españa deben respetar debemos respetar

y el voto de todos los ciudadanos esto es como digo el abc de la democracia pero conviene recordarlo por lo demás que este parlamento

que no tiene o que llegue a decir que euskadi tiene derecho a la autodeterminación o que el pueblo vasco puede decidir su futuro

es simple y llanamente papel mojado no tiene valor jurídico relevante no tiene ningún valor porque los hechos son los que he señalado antes todos los proyectos políticos democráticos pueden defenderse

para su plasmación definitiva la legalidad vigente y los procedimientos establecidos eso sí me parece fundamental y esto es importante que cada partido político diga qué quiere cuándo y cómo pretende alcanzarlo y en este punto evidentemente hay que señalar otra vez

qué es exactamente lo que quiere con quién pretende llevarlo adelante y cuáles son los plazos que se marca por lo tanto claridad

en el caso del partido nacionalista vasco que históricamente ha jugado siempre a dos bandas dicho esto que es de primero de democracia

sobre las propuestas de otro a mí por ejemplo pedir la independencia de euskadi en lugar de defender una europa unida sin fronteras interiores me parece y algo además muy perjudicial para los ciudadanos vascos considero que es mejor derribar fronteras que levantarlas

ampliar los espacios de convivencia que achicarlos considero que es una inmensa pérdida de tiempo discutir sobre identidades colectivas en lugar de sobre derechos

las necesidades reales del conjunto de la sociedad en relación a la propuesta independentista de eh bildu

que es profundamente antidemocrática y claramente ilegal no solamente eso sino que además es absurda en el mundo globalizado

de ciudadanos libres que queremos construir nosotros preferimos seguir trabajando y seguir reivindicando

de ciudadanos libres iguales una europa sin muros ni fronteras ni barreras interiores una europa con unas instituciones más transparentes y más democráticas

y una europa más disponible más dispuesta más preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y más capaz de mejorar

hoy ser un pequeño estado país o territorio tiene muchas más desventajas que ventajas

de algunos en las que ni siquiera merece la pena entrar

aspiramos a vivir en una europa unida diversa solidaria donde quepan los sentimientos de todos y donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones y desde luego más social más igualitaria y más solidaria en fin si a los nacionalistas

intervención nos queda recordar la primera es decir nos queda recordar la legalidad vigente y el estado de derecho y la constitución española y nos queda recordar que el modelo territorial del estado lo decidimos entre todos los ciudadanos españoles y que la ciudadanía

y que la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos y que el derecho a la autodeterminación o el derecho a decidir que plantean los nacionalistas en ninguna constitución democrática del mundo puesto que es prácticamente imposible convencer a los nacionalistas nos centramos en nuestra enmienda

en recordar qué es lo que dice la constitución qué es que dice la legalidad vigente qué es lo que dice

en las que se basa nuestra democracia pido por lo tanto a todos los grupos que voten a favor de la enmienda